violencia machista y de género no está erradicada en euskadi y no es un consuelo para nuestro grupo político que este

está muy extendido la señora urrea nos ha dado datos de violencia de género en la unión europea el señor maneiro

en el caso de españa mientras exista violencia de género estamos obligados a establecer políticas de prevención y políticas para

el mismo martes hace dos días se encontraron los cadáveres de dos

asesinadas por la pareja de la primera y desaparecidas desde el mes de junio

precisamente el día internacional contra la violencia de género un día consagrado a denunciar a rechazar

que es consciente de un problema social y que las instituciones y sus representantes de forma unánime asumimos la importancia de luchar contra esta lacra y es verdad es un día señora urrea

y lo simbólico es importante usted misma hablaba en su intervención de la violencia simbólica pues la representación simbólica que supone vernos a todos unidos contra la violencia de género un día señalado

mucha importancia por eso creo que no deberíamos hoy en este debate dar ni un paso atrás en esta imagen de unidad y determinación pública institucional

que ha conseguido representar un gran liderazgo social un liderazgo que suma

y voluntades individuales para que los ciudadanos no se mantengan al margen de este problema lo conozcan mejor

van a poder ayudar a las personas que lo sufren si miramos las encuestas no hay ninguna encuesta en el país vasco que pregunte a los vascos que nos pregunte cuáles son los principales que tiene la sociedad

es más si preguntas a los vascos y a las vascas cuál es el problema

tampoco la violencia de género es una por suerte porque sería mucho más dramático si esto fuera así pero si vemos con retrospectiva

y cuando se pregunta expresamente por ella sí vemos lo que se ha avanzado y solo hay que revisar los estudios los ingentes estudios que hay sobre este tema en la documentación

mucho y eso es lo que he echado de menos en su intervención señora urrea son muchas declaraciones y muchas manifestaciones desde hace mucho tiempo

inveterado y evidente si para erradicar la violencia de género más medios o más recursos o más medidas está claro que es algo discutible pero son matices en el debate matices entre partidos que seguiremos teniendo que seguiremos trayendo a esta cámara como es lógico también en los debates presupuestarios que vamos a tener pero

que hay en materia de lucha contra la violencia de género nuestro grupo no ve la necesidad en este momento

una ponencia ad hoc por desgracia creemos que no es la panacea al problema de la violencia de género no ha pasado tanto tiempo desde que este parlamento que tampoco ha hecho usted mención a lo mismo haya trabajado en ponencias sobre violencia de género seis años me dirá usted igual es mucho tiempo pues no lo sé no sé si han leído si no les animo a que lo hagan

es verdad que íntegra de mujeres incluso la letrada salvo en la segunda legislatura siguiente

y hay muchas resoluciones compartidas y no es un trabajo

ya creo que lo que se haya que hacer hay que hacerlo avanzando en lo que ya se está trabajando la enmienda transaccional

tiene tres puntos que abarca todo aquello en lo que creo que los grupos encontramos un denominador común y hemos evitado deliberadamente los matices las diferencias

contra la violencia de género que sí que es simbólico pero lo simbólico

no me parece el mejor momento para que se escenifique ninguna diferencia por eso en la enmienda se habla de acuerdos interinstitucionales de colaboración de políticas integrales

de jóvenes no desenfoquemos hoy esa foto porque tan solo dos días después esa foto de unidad que se trasladó en tantas y tantas escalinatas de ayuntamientos

no se merece que hoy demos y traslademos otra impresión

transaccional porque quiere provocar esa estampa de unidad sin menos cavar señora urrea la buena intención que seguro

buenas tardes los socialistas y las socialistas vascos estamos muy preocupados diez años después de aprobar la ley integral

las denuncias aumentan y aumentan las retiradas de las denuncias nos preguntamos qué está pasando cómo es posible que hoy diez años después se está relajando la presión institucional cómo los jóvenes tribalizan el desprecio a la mujer cómo es posible que haya menos hombres que temen a la ley y más mujeres temiendo a sus parejas porque la ley integral

supuso una apuesta inequívoca por la lucha contra la violencia de género por la defensa decidida de la ciudadanía en las situaciones de máxima vulnerabilidad aquella norma dio un tratamiento integral y sistemático

esa visión integral pionera y modélica supuso un antes y un después en la lucha contra la violencia pero esta década se divide con nitidez

los siete años de avance fueron de la mano de un gobierno socialista decidido

a trabajar por la sociedad la ley integral está hoy amenazada por la responsabilidad de un gobierno central

de los discursos políticos y la violencia de género de sus prioridades el de las mujeres sigue siendo un colectivo más vulnerable de nuestra sociedad

y perjudicado con tantas reformas impuestas la reforma laboral le sigue haciendo dependientes de sus parejas y la economía doméstica las tasas judiciales limitan el accesos a su defensa

la reforma local desmantela los servicios de apoyo a las víctimas la laminación de la ley de dependencia

atenciones en el hogar aumenta su dependencia económica limitando sus posibilidades de tener una vida propia la ley de educación hace desaparecer la asignatura de educación para la ciudadanía clave en la prevención de la violencia de género en estas escuelas

de formar a los futuros ciudadanos y ciudadanas en valores como el respeto y la dignidad de las personas y en la igualdad

en las escuelas se elimina la mejor medicina contra la violencia de género la prevención podría estar enumerando multitud de pasos atrás que ha aplicado el gobierno del partido popular en cifras

en un treinta y tres por ciento en esta legislatura y en políticas contra la violencia de género se han reducido un veintidós por ciento no podemos permitir tanto recortes y recursos y medidas dirigidas a la población más vulnerable

cuando terminar con esta violencia es un problema de estado

una evaluación de nuestras políticas públicas de las que tenemos que hablar si queremos que de un debate parlamentario salga algo más que una mera declaración de intenciones pero no podemos quedarnos en analizar lo hecho por el gobierno de españa aquí en este parlamento nos corresponde

y en esta legislatura se han introducido cambios que creemos que también están perjudicando toda esa actuación integral

diez años una de las principales novedades para hacer variable esta ley fue la creación de una dirección de atención a las víctimas de violencia de género

entendió que para ser coherente con estas políticas integrales había que contar con una actuación política integral

en otros casos las víctimas se acogerían con mayor eficacia si una dirección coordinaba las diferentes actuaciones de la administración eso lo hizo desaparecer el gobierno del señor urkullu

para reconsiderar la situación podemos crear ponencias podemos emplazar análisis y podemos pedir a emakunde que se reúna con colectivos nada de eso sobra pero nos urge ser más eficaces eso no puede esperar

la que existía hace dos años y que evitaba a las mujeres agredidas peregrinar por departamentos

en lugar de encontrar el recurso con el que protegerse de su agresor

algo pasa si vemos que las mujeres dejan de denunciar o si cuando lo hacen acaban por retirar la denuncia

y encontrarse en casa con su agresor también en esta evaluación de políticas insistimos en que se valore

porque con su actual modelo para realizar su labor de protección extiende la responsabilidad al conjunto de la organización y las unidades especiales deben tener la cabeza y la organización centrada en las víctimas

y en sus miedos por lo tanto hay que hacer una evaluación y una mejora de los protocolos de actuación en torno a las políticas actuales

debemos transformarlas en políticas efectivas y no debemos bajar la guardia

hay que intensificar la formación permanente para la construcción de una sociedad sin violencia machista

por eso hemos participado en el acuerdo de la enmienda transaccional porque nos parece fundamental tener un acuerdo tener un consenso

a ver si desaparece y por lo que podemos trabajar para eliminar la violencia machista el punto que hemos presentado y que hemos contribuido a un esfuerzo para acogernos y poder integrarnos en esta enmienda

hacer el recabar que la juventud la juventud es importante nos parece importantísimo que hemos realizado sobre las preocupaciones de prestales atención

entre la población más joven con el fin de sentar las bases en una sociedad futura con respeto y con tolerancia en el que estemos trabajando

que queremos sacar en este debate que se celebra oportunamente entre el día veinticinco de noviembre día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer

día de los derechos humanos buscar la eficacia en la lucha contra la violencia de género es defender uno de los derechos humanos

nos hemos marcado como guía de actuación la lucha contra la desigualdad

afecta de forma especial a las mujeres y entre estas y aquellas que sufren las amenazas constantes entre las paredes de sus hogares solo esta

no nos conformemos con un acuerdo político la violencia machista vulnera todos los derechos humanos y es un importante obstáculo para el progreso de las mujeres en todos los ámbitos de la vida debilita la salud de las mujeres anula sus expectativas de educación y trabajo productivo

de pleno derecho de la sociedad la violencia machista pues además de injusta tiene unos costes sociales sanitarios y económicos muy elevados

es buena ocasión para que imaginemos un día sin violencia contra las mujeres y las niñas un mundo en que la igualdad el respeto

todos debemos tener un papel que cumplir debemos poner todo de nuestra parte para poner fin a la violencia contra las mujeres

también en euskadi necesitamos urgentemente que las políticas de igualdad vuelvan a ser prioritarias debemos multiplicar urgentemente esfuerzos para hacer frente a la violencia de genero con medidas como la recuperación de la ventanilla única

en euskadi y hacer una evaluación permanente sí no somos suficientemente eficaces realizar a tiempo hoy no somos suficiente eficaces

nuestras bases de ideología en la lucha integral en esta batalla urge la reacción y la mejor forma de combatir la violencia de genero
es defender la igualdad muchas gracias eskerrik asko fresno andrea euzko abertzaleak

intervención respecto al compromiso de este gobierno y de todos los grupos que formamos este parlamento indarkeria matxista gure gizartetik

tal y como han manifestado los representantes de los otros grupos que me han precedido en el uso de la palabra hemos firmado una enmienda transaccional que entendemos que es muy completa

instituciones asociaciones a colaborar entre ellos y a continuar reforzando su trabajo en el análisis y puesta en marcha de medidas para responder a las necesidades detectadas en dicho análisis así como garantizando los recursos necesarios creo que todos los grupos firmantes hemos sido muy generosos al dejar de lado las flamas partidistas al menos en el papel y transar una enmienda como esta

dentro de las posibilidades de las instituciones y su colaboración con otras y con diferentes agentes y esperemos que eficaz con la mayor humildad posible lo digo a fin de terminar con esta lacra social aunque señora fresno veo que no podía dejar de la oportunidad de recordar

de la dirección de atención a las víctimas de violencia de género en lo que llevamos de legislatura ha sido muy recurrente en el discurso de su partido por lo que le vuelvo a explicar

se ha mantenido la prestación de todos los servicios de atención y asistencia por parte

a excepción de la directora y la asesora que cesaron en el cargo emakunde realizó la revisión y el análisis de las funciones recursos y servicios que asumió la dirección a través de la información remitida y explicada

en materia de violencia contra las mujeres a partir de este análisis se elaboró una propuesta sobre la reintegración de dichos servicios en la actuación del gobierno vasco

el trabajo que se había venido desarrollando todos estos años su grupo conoce todos estos cambios han sido exquisitamente detallados en varias comparecencias

en este tema y avancemos hacia delante unidos en la mejora de estas funciones y de estos servicios es por ello

analizando muy por encima el texto transado me gustaría reseñar varios aspectos recogidos en los tres puntos en el primer punto hacemos mención

interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y violencia sexual que adopta sus resoluciones de modo unánime como saben el segundo acuerdo interinstitucional se firmó en el año dos mil nueve

adecuarlo a la nueva situación esto es la nueva legislación en materia de igualdad

y también para completar los protocolos acuerdos de colaboración y otro tipo de instrumentos jurídicos contempla compromisos y protocolos en colaboración con las áreas de salud seguridad justicia áreas sociales educación diputaciones forales eudel colegios de abogados consejo vasco de la abogacía consejo médico vasco es un acuerdo marco que cada año aprueba un informe de seguimiento y evaluación que se recoge en ese informe pues que todas las instituciones implicadas

y aquí quisiera mencionar al movimiento asociativo porque si bien no se recoge expresamente al igual que la figura del ararteko la colaboración con ellos es continua

en el segundo punto instamos a emakunde a que en colaboración con las entidades implicadas en la materia así como con organizaciones expertas y representantes del movimiento asociativo

integral de las políticas actuales contra la violencia hacia las mujeres y proponga las medidas adecuadas para responder a las necesidades detectadas en dicho análisis así como a los ámbitos de mejora identificados en la evaluación que se citaba en punto primero

puntutik esaldi hau azpimarratu nahiko nuke prestando especial atención a la intervención dirigida

entre la población más joven con el fin de sentar las bases de una sociedad futura de respeto y tolerancia bortxakeria matxistaren eragina

urrea respecto a su propuesta de crear una ponencia espero que me dé tiempo y sino seguiré en el segundo turno no siempre es mala idea en muchos casos ha funcionado para madurar y analizar temas que entiendo no habían sido previamente abordados pero en este tema y aquí en euskadi creemos que esa fase está superada

el equipo de expertos y las dinámicas ya establecidas para que realmente el resultado sea inmediato la constitución de la ponencia en este caso no aporta valor añadido

sin embargo podría suponer demorar en el tiempo poner en marcha las medidas que seguramente serían las que hoy adoptamos aquí no hay tiempo suficiente para explicar

con los mecanismos y herramientas ya existentes que son los que hay que reforzar y mejorar

apoyando esta enmienda en cualquier caso le invito a que

podría resumir las intervenciones de hoy

en el parlamento vasco es una materia que preocupa pero que no ocupa

a la responsabilidad política que tenemos por ello voy a volver

que incorporen la creación de la ponencia a la enmienda transaccional porque como lo he dicho antes supone en primer lugar contar con la participación activa de todos los agentes que tenemos que estar implicados

de primer orden para la sociedad así nos lo están reivindicando no hay más que ver el veinticinco de noviembre como hago además mías las palabras del movimiento feminista estamos hartas

pero de no poner en realidad la violencia machista como una política de primer

social de primera magnitud una ponencia que nos va a permitir estudiar a fondo cuál es la situación actual cuál es el contexto actual valorar las políticas actuales las que sean positivas así serán y en otros casos

la creación de nuevas políticas que mejoren actualmente los protocolos la coordinación interinstitucional el empoderamiento de las mujeres la formación continua

compartiendo las vivencias conociendo muchas otras políticas que nos pueden aportar

para llevar a cabo en materia de violencia machista en la enmienda transaccional que plantean desde luego mejora sustancialmente las enmiendas iniciales y en primer lugar tengo que decir que es incompatible una propuesta que no destine los recursos

socioeconómicos adecuados difícilmente podremos

la violencia machista transitar hacia unas vidas libres de violencia machista pero también diré que no es incompatible con la creación de una ponencia no es incompatible todo lo contrario es responsabilidad institucional

que dar carácter de prioritario incluir la ponencia y voy a apelar al eslogan de emakunde del pasado año supone

y supone restar precisamente lo que va a suceder hoy aquí y es que no van a aprobar la ponencia parece que hoy es el pleno las ponencias fracasadas

con ello y por ello queríamos la aprobación de esta ponencia porque nos parece fundamental y urgente y partir de conceptos claves

que nos parece fundamental y es que el segundo acuerdo interinstitucional

parte de un concepto completamente desvirtuado completamente obsoleto que nos habla de violencia doméstica y violencia sexual tenemos que partir incluso de una reconceptualización de la violencia

revisiones al respecto nos parece que en relación

que está muy bien pero tenemos que avanzar es momento de dar un salto de ir más allá y verdaderamente tener la suficiente cordura política como para situar a la violencia machista como un problema de primer orden político

esta es una ocasión clara para mostrar a la sociedad nuestra responsabilidad como parlamento vasco

a la consejera de seguridad y al consejero de empleo y políticas sociales en relación al consejero de empleo y políticas sociales hemos podido observar cómo la pasada semana diversas organizaciones sociales se plantaban frente al gobierno vasco decir que con las políticas de empleo y políticas sociales sumergen a las mujeres en violencia estructural violencia machista

una orden de alejamiento en vigor lo cual depende de la voluntad de los jueces no de las mujeres y en el caso de que tengan hijos a los hijos una denuncia para poder acceder a ayudas sociales no es suficiente es absolutamente vergonzoso que estemos hablando de la preocupación que tenemos por la violencia machista y no abordemos de manera estructural este tema

como sociedad verdaderamente de una manera seria de una manera concisa vamos a crear esta ponencia es momento de actuar y pasar a los hechos estamos hartas

que luego no se materializa estamos hartas de que nos sigan matando y sigan acabando con nuestras vidas por el simple hecho de ser mujeres es momento de pasar a la acción

sí gracias señora presidenta me ha sorprendida

de parte de la intervención del grupo socialista más que nada porque es verdad que lo que se vota aquí son acuerdos en este caso una enmienda transaccional y no se votan intervenciones porque sino me lo habría puesto usted muy difícil para firmar nada con el grupo

yo entiendo que es una tentación a la que ningún representante

no se reprimen que haya una dosis siempre inherente a cualquier intervención para hacer oposición al gobierno de españa pero bueno intenten ser diputados en la próxima legislatura a lo que les animo bien violencia domestica en euskadi malos tratos

del parlamento que tuvo el honor y el mérito de recibir el premio de investigación realidad social vasca en dos mil tres una publicación

silvestre la anterior directora de emakunde independiente una profesional que

no fue la responsable de las políticas de violencia de género en el partido socialista

y menciono todo esto porque creando la ponencia que es a lo que no estoy de acuerdo se puede dar la

que no se ha hecho lo suficiente en materia de violencia de género que

y las vascas no nos hemos preocupado por este tema y yo creo que no es justo porque es cierto que hemos sido

y además hemos sido también referente no solo en el ámbito político institucional también en el académico yo creo que fuimos una de las primeras comunidades que incluso hizo programas contra para

es decir siempre hay que estar renovando y actualizando y detectando nuevas formas de violencia machista pero para ponernos de acuerdo y para transmitir unidad evidentemente tenemos diferentes políticas pero no podemos insistir y eso es algo que también hay que superar decía la señora arrizabalaga que hay fases que

y las del conocimiento de esta realidad social información sobreinformación lo que hay que hacer es gestionarla convertirla en conocimiento y trasladarla a políticas pero yo creo que la fase de ponencia yo no digo que en el futuro no haya que recurrir otra vez a ello

no sería la panacea pero insisto

para poder hacer de la imagen del pasado martes algo mucho más creíble y es pensar que algunos lo tienen muy interiorizado

tienen un plus de autoridad y legitimidad si vienen desde la izquierda o si vienen desde partidos que se reclaman feministas y eso tampoco es así

una y tantas veces sea necesario sobre recursos medios protocolos o que cuestionemos la gestión concreta de programas de políticas

la determinación de todos contra la violencia de género ya digo que se puede discutir si unos programas son más adecuados o no

hacer políticas más coordinadas pero

no le he escuchado a la señora urrea en esta cámara reconocer todo lo que se ha hecho y yo creo que lo que usted ha definido en un principio hablando de que era una utopía puede que sea una utopía puede que ahora a usted le parezca que sea irrealizable radicar del todo la violencia de género lo que yo

es que no es ninguna quimera porque solo hay que mirar la vista atrás para ver como estábamos hace

diez veinte años y todo lo que están haciendo las instituciones con mayor o menor acierto con nuestros matices nuestras discrepancias pero creo que si hay un tema en el que realmente

públicamente y que eso ha arrastrado y ha liderado a la sociedad este ha sido uno gracias eskerrik asko ruiz andrea

nosotros los socialistas no miramos al espejo retrovisor miramos hacia adelante y defendemos las políticas que han funcionado

que pretendían mejorar las políticas y que funcionaban eso es la pena señora urrea a ver nosotros no nos parece

una ponencia porque creemos en este momento que se deben tomar medidas medidas más concretas nosotros hemos acordado en la enmienda transaccional que hemos participado

el partido socialista hemos contribuido haciendo un esfuerzo consideramos que necesitamos acuerdos para seguir trabajando

por eso hemos propuesto medidas concretas por eso trabajamos pensando en las medidas concretas y ponerlas en funcionamiento aunque realmente está enmienda no recoge todas las carencias que vemos y necesidades y objetivos que tenemos marcado en nuestro trabajo los socialistas nos parece de importancia las aportación que hemos realizado sobre la preocupación

de atención en la intervención dirigida a la prevención y la educación entre la población más joven con el fin de sentar las bases

en el respeto y en la tolerancia nuestra preocupación no pretende extender catastrofismos los socialistas

no diremos que los fiscales han dejado de hacer su trabajo con las víctimas de la violencia machista ni que emakunde no tenga esta cuestión entre sus prioridades ni que nuestros educadores no estén preocupados porque no ven lo que

no se atiendan a las mujeres agredidas ni que

que es ayudar a estas mujeres no décimos eso decimos que para la mujer

se siente amenazada es mejor acudir a una única ventanilla para que sea la administración la que arregle sus problemas de vivienda sanitarios psicológicos laborales en lugar de peregrinar por cada departamento del gobierno creemos que eso es eficacia

el pasado año por estas fechas centramos nuestras preocupaciones en el incremento de las agresiones sexistas incluso entre menores y se puso en marcha un programa específico de actuación entre emakunde y eudel estamos asistiendo revitalización de estereotipos que creíamos superados en este mismo parlamento hemos emprendido iniciativas para paralizar la televisión pública un programa de citas donde la mujer se convertía en objeto y trofeo a una cuadrilla

en los mensajes sexistas en la publicidad aumenta el número de jóvenes que ven en la violencia un instrumento para conseguir un objetivo y según emakunde

fueron víctimas de violencia de género hasta doscientos cincuenta y cuatro de chicas menores

han llegado a sufrir en nuestro entorno y siguen sufriendo a la vez el observatorio como la violencia de género ha contabilizado un incremento

pero a lo largo de este período se ha detectado que hasta una de cada cinco

por todo ello en un ambiente en el que aumentan quienes tienen una opinión de la mujer como mentirosa se extiende la idea de las denuncias en falso

con urgencia sin descartar nuevos foros de reflexión ponencias emplazamientos

hay que trabajar en lo estratégico pero hay que trabajar en la urgencia de esas mujeres que dudan a quién acudir que sienten que no se les atiende

para encontrar una salida los datos son tozudos

eskerrik asko berriro ere mahaiburua señora fresno este gobierno

en lo que al caso de la dirección de la atención a las víctimas de violencia de género se refiere únicamente adecuó y mejoró la situación señora urrea usted no ha entendido nada es que

vivimos usted desprecia lo que se ha hecho aquí en euskadi durante tanto tiempo tanto trabajo tanto esfuerzo todo lo que se ha logrado y con ese discurso tan radical y tal lejana a la realidad al menos ante mi grupo le resta credibilidad comentabas

que falta dentro de emakunde que es casi inexistente que no se tiene en cuenta quería comentarle al respecto

usted conoce la comisión consultiva que es el órgano de interlocución directa con las asociaciones y sus comisiones en cada provincia yo no sé si usted ha entrado en la página web de emakunde le invito a que lo cliquee

adscritos uno de ellos es la comisión consultiva de emakunde

como órgano adscrito a dicho instituto que tiene por objeto ser un cauce de comunicación entre las asociaciones de mujeres y el instituto para posibilitar un espacio común

críticas y aportaciones a las políticas de igualdad desarrolladas en la comunidad así como un instrumento para fomentar y dinamizar el movimiento asociativo

acceda y verá que lo que dicen no es verdad o acaso el trabajo que estas asociaciones hacen a usted no le vale

que se trata de un tema este prioritario para este gobierno eta baita